egin diren eta esplikatuko dizkizut desde el año dos mil siete hasta el año dos mil nueve en los programas gaitek innotek etorgai y saiotek el conjunto de la empresa ha recibido

y en el período dos mil diez dos mil doce en los mismos programas gaitek innotek etorgai y saiotek

es decir se trata de subvenciones concedidas ayudas y subvenciones concedidas a incoesa en el ámbito de la tecnología

y en muchos casos además como proyectos en colaboración con importantes empresas del entorno se puede apreciar por tanto que desde ese año que consideramos desde el año dos mil siete

lo cual permite afirmar que existe un importante proyecto dentro del departamento de ingeniería de productos y nuevos desarrollos

de tecnologías para la transmisión y distribución eléctrica sita en derio

consolidado y con capacidad de actuación con respecto al posible caso de deslocalización el tratamiento que vamos a realizar vamos a hacerlo de forma estricta y de común acuerdo con la diputación foral de bizkaia

que comentaba en primer lugar desde luego han sido trabajadas

de subvenciones no se puede poner en duda por otra parte en lo que se refiere a las actuaciones para negociar con los y las trabajadoras se ha trabajado en dos ámbitos según

empleo y políticas sociales por una parte la intermediación para intentar solventar el conflicto planteado que como usted bien dice no está dando los resultados adecuados sin embargo se mantiene abierta la línea de trabajo y por otra parte en el juzgado de lo mercantil número dos

con fecha veintinueve de julio sobre el traslado colectivo y modificación sustancial de condiciones del trabajo de los trabajadores de la sociedad magnéticos bedia

por tanto esas son las dos líneas de trabajo que se han llevado acabo desde el departamento de empleo y políticas sociales y vamos a continuar intentando llegar a ese acuerdo con los trabajadores

en castellano por favor zenbatetan hitz egin behar izan dugu

es condición necesariay una de las principales claves no la única pero sí la principal y más decisiva

los factores que inciden en el uso del euskera son diversos la densidad de vasco hablantes la competencia relativa en euskera de los vascohablantes con respecto al castellano

el contexto sociolingüístico la propia voluntad del hablante

protección de los derechos lingüísticos la dimensión de la comunidad vascohablante y la atractividad del euskera entre otros recientemente hemos presentado en la comisión de cultura política lingüística juventud y deporte el plan de acción para la promoción del euskera

dicho plan constituye el documento el marco general para el desarrollo de medidas de política lingüística necesarias para garantizar la normalización social del euskera

de las dos lenguas oficiales en la comunidad autónoma vasca es el objetivo de la ley del euskera es nuestro objetivo solo alcanzando un bilingüismo individual y un bilingüismo social equilibrado se puede hacer realidad la garantía de la opción lingüística con plena libertad

la construcción de una sociedad en la que nadie nunca y en ningún sitio se ha discriminado por cuestión de lengua hizkuntza eskubideak mundu moderno

este sistema supone que los salarios del personal docente son abonados directamente por la administración al profesorado en nombre del centro concertado sin embargo esta responsabilidad no es absoluta

cuantificados en la ley de presupuestos generales de euskadi la reducción de los módulos económicos por vía presupuestaria o por imposiciones legales como ha sido el caso

las posibles alteraciones salariales que se puedan producir mediante pactos colectivos entre empresas y trabajadores solo podrán ser asumidas por la administración en cuanto no superen el citado limite legal ezin ukatu

en cuanto a los convenios colectivos instando a la negociación entre las partes

buenos días buenos días señora consejera recientemente usted ha comparecido en la comisión parlamentaria correspondiente para explicar la posición del gobierno y de su departamento ante una denuncia del sindicato sobre el posible amaño de un concurso para adscribir a la policía foral de la diputación de bizkaia

ante una sentencia emitida el pasado mes de septiembre por el juzgado de lo contencioso administrativo número dos de vitoria

el nombramiento de treinta comisarios efectivamente en esa usted dio una serie de explicaciones y pudo exponer la posición de su departamento y del gobierno bien señora consejera miremos al futuro

dotándose de sistemas más trasparentes en los que la evaluación de meritos y capacidades

queríamos conocer su opinión señora consejera en relación a qué debe hacerse para evitar estas situaciones en el futuro y cómo va a actuar de ahora en adelante

bien señor maneiro la transparencia no es una

de denuncias sobre rumores sobre opiniones interesadas o informaciones sin ningún tipo de contraste

trabajan se acuerdan y se aprueban y es su aplicación

el mejor ejercicio de transparencia en este caso la ley de policía vasca es la única referencia válida que fija los procedimientos de promoción interna y las adscripciones a comisiones de servicios y esa es la base legal regulada para el ejercicio practico de la transparencia esa es la base legal que

la aplicación de los procedimientos de promoción interna y comisiones de servicios evidentemente como usted dice todo es mejorable efectivamente pero como ya le explique hace una semana en la comisión correspondiente donde usted tuvo la oportunidad de escucharme

únicamente ha sido cuestionados dos por sentencia únicamente dos en más de treinta y uno años así pues

hemos conocido la sentencia cuatrocientos treinta barra dos mil trece del pasado día dieciocho de julio del tribunal superior de justicia del país vasco y sobre la que no cabe recurso alguno que señala algunos aspectos que tumban la forma de concebir

señora consejera usted conoce esta sentencia usted conoce el contenido de esta sentencia

las leyes y las sentencias judiciales y también esta última sentencia que viene a decir lo siguiente la comisión de servicios no es un sistema alternativo al concurso de méritos la administración no puede optar entre el concurso de méritos y la comisión de servicios como sistema de provisión

alternativos y algunas cosas más que obviamente no me da tiempo a leer en todo caso señora consejera teniendo en cuenta lo que esta sentencia dice que supongo que usted la conoce y la habrá leído es usted consciente que el chollo que tenían ustedes

y que van a tener que incluir criterios de evaluación de méritos y capacidades en las diferentes provisiones de puestos de trabajo qué tiene previsto hacer con los cerca de

a día de hoy en comisión de servicios de manera irregular por lo que dice esta sentencia

de acuerdo con la resolución judicial que yo le cito y finalmente señora consejera es usted consciente de que se debe sentar con los sindicatos para negociar de una vez por todas la reestructuración de la ertzaintza un nuevo modelo y en todo caso señora consejera si se ha leído la sentencia qué opinión le merece y que repercusiones va a tener esto para el gobierno vasco para el departamento

solamente en dos ocasiones han sido cuestionados por sentencia una una

en un proceso de promoción interna por incluir una reserva en favor de las mujeres que seguramente usted y yo estamos de acuerdo pero efectivamente no cumplía con la ley

esa convocatoria y otro caso más reciente efectivamente y usted lo ha comentado las bases de la convocatoria para el proceso selectivo de ascenso a comisarios

directora de la academia vasca de policía y emergencias es verdad ha sido declarado nulo en primera instancia esos dos procesos en más de treinta años

en cuanto a la relación de comisiones de servicios a los que usted me hacía mención efectivamente

está perfectamente tasado en la ley de policía cuáles son los principios que hay que aplicar

ya le comenté también el pasado viernes en la comisión y le expliqué

que los límites de la transparencia los señaló ya la sentencia de quince de junio de dos mil nueve la sentencia que emitió el juzgado de lo contencioso administrativo número uno de bilbao que dejaba bien claro que una cosa son las comisiones de servicios de carácter general para la cobertura de puestos de trabajos de la plantilla de la ertzaintza y otra muy distinta

para la cobertura de necesidades específicas puntuales y temporales en estos casos la agilidad del procedimiento responde siempre a la necesidad de satisfacer las necesidades excepcionales que se dan en los servicios de la ertzaintza por tanto usted habla de nuevos en qué tiempos perdón me ha preguntado

relaciones con los sindicatos demos tiempo al tiempo y cuando efectivamente tengamos una propuesta concreta de remodelación de reestructuración de la ertzaintza

yo tengo una relación constante y continua con los sindicatos por tanto no se preocupe que tendrán esa información a su debido momento eskerrik asko

señor consejero el uso de cigarrillos electrónicos se está extendiendo en nuestro entorno y en las últimas fechas hay una relevante expansión de negocios de venta de este producto

especialmente como método sustitutivo del tabaco tradicional sin embargo la sociedad española de neumología y cirugía torácica

sobre estos dispositivos ya que contienen sustancias idénticas a las que lleva el cigarrillo tradicional y por tanto tienen potencial cancerígeno de hecho

además la unión europea trabaja en un borrador de directiva de forma que los dispositivos electrónicos con una cantidad reducida de nicotina puedan ser vendidos solo en las farmacias además de extender para el resto la prohibición de fumar

por tanto existe en este momento muchas dudas para los ciudadanos

hay muchas dudas también sobre su efecto en quienes comparten espacios con los que exhalan estos vapores del cigarrillo electrónico y muchas dudas también para emprendedores

pretendiendo vender un producto que tal vez en poco tiempo pueda ser muy limitado en su uso por ello consideramos necesario que el responsable de salud y consumo
ofrezca su criterio en torno a la regulación de los cigarrillos electrónicos eskerrik asko

egun on en relación a la utilización del cigarrillo electrónico como sustitutorio del tabaco

está en línea con la recomendaciones de la organización mundial de la salud al respecto quien con carácter general desaconseja el uso de cigarrillos electrónicos estamos a la espera de la futura directiva europea en la que como usted ha señalado la unión europea ya trabaja

ni el estado español cuentan con legislación específica para regular este tipo de productos nos encontramos pues en un impasse que esperemos pronto cerrada la norma que actualmente

mientras tanto el departamento de salud a través de la dirección de salud pública y adicciones y de kontsumobide estamos recabando analizando

la información disponible al respecto preparándonos así para aplicar la futura directiva europea que será como conocen de obligado cumplimiento

el gobierno vasco debe de tener criterios propios y tiene margen para hacerlo de hecho

fue la que en el uso de sus competencias reguló el consumo del tabaco en lugares públicos

fue una tramitación que provocó un intenso debate político todavía podemos hoy recordar aquellos publireportajes de los locales insumisos de aquellos taberneros que rompían a hachazos las maquinas expendedoras

el resultado es que tomar la iniciativa fue bueno adelantarse fue bueno tener un criterio defenderlo y ganarse los acuerdos para hacerlo posible fue bueno muy bueno para la salud de los vascos es verdad que la incidencia del consumo del tabaco permite hoy todavía un recorrido de mejora importante

de los espacios compartidos además de constatarse un generalizado

que sin perder de vista la norma general que pueda establecer bruselas trabaje

para establecer los límites que sean necesarios para preservar la salud general que desde el departamento de salud de informe también a los consumidores bien de los riesgos bien de las dudas

que se trabaje también con los establecimientos que venden estos cigarrillos y los que

iniciar su venta para que colaboren en ofrecer una información precisa y para ofrecerles también a ellos datos sobre los pasos a seguir por el gobierno y la forma en que puede afectar a su actividad comercial en definitiva

instarle señor consejero para que tome decisiones aclaratorias para el mercado y de protección para la salud de los ciudadanos vascos muchas gracias eskerrik asko

salud pública y kontsumobide realizan su labor de control pero la situación actual es la misma que ha venido siempre legislación autonómica ni estatal y estamos a la espera de la directiva europea porque puede ir en varios sentidos lo puede considerar un producto farmacéutico

orduan además de las tareas de vigilancia ya apuntadas y a la espera de la norma europea nuestro criterio como ya le he dicho está en sintonía

y desaconsejamos su utilización desde luego como administración compartimos su preocupación y compartimos la preocupación expresada por las sociedades científicas de prestigio que ha mencionado la sociedad española de neumología y cirugía torácica

a día de hoy en cualquier caso no hay una evidencia científica sobre los riesgos de estos productos

que no tienen ningún efecto beneficioso para la salud y no deben catalogarse como ayuda para dejar de fumar herritarrek

señor consejero volvemos a abordar un asunto reiterativo y ya me atrevo decir que hasta incómodo para usted porque los acontecimientos actuales

que sí que es un asunto que merece la atención de quienes estamos en esta cámara señor consejero por eso y por nada más los socialistas hemos mantenido vivo este tema en las sesiones parlamentarias se manifestaban hoy mismo los trabajadores de fagor

incertidumbre y no puede dejar de mostrar en nombre del grupo socialista una profunda preocupación por la situación actual de fagor

desde aquí para ellos toda la solidaridad del grupo socialista pero señor consejero no podemos obviar

y hablo de quienes compraron de buena fe y según denuncian de forma engañosa las aportaciones financieras subordinadas y que hoy deben ponerse

también sienten desamparo e incertidumbre y le diré señor consejero que el informe de la comisión nacional del mercado de valores emitido en el mes de marzo en la página número siete

que compraron estas aportaciones financieras subordinadas y en la página catorce refleja el saldo vivo al mes de marzo

en eroski mantienen treinta mil seiscientos veintiuno personas

mesedez casi cuarenta mil personas ahí le queda cuarenta mil personas afectadas

entiende señor consejero por qué nosotros propusimos eliminar una previsión legal que

propuesta que ha sido desestimada por esta cámara pero que también el gobierno vasco ha rechazado

o arbitral eso lo pone el informe esto entra en contradicción con lo que apuntó la directora de kontsumobide

en esta cámara que abogaba por una solución vía mediación por ello le preguntamos cuáles son las razones

y kontsumobide en relación con la vía de solución posible para todas las personas afectadas por aportaciones financieras subordinadas eskerrik asko

solidaridad con el conjunto de la corporación de mondragón y especialmente con los cooperativistas de fagor por ello quizás no era el día a nuestro entender más apropiado para preguntar por las subordinadas pero en cualquier caso

como base un texto literal de un documento elaborado por el gobierno en relación a la toma en consideración de una proposición de ley en concreto la uno barra dos mil de veintinueve de junio

de euskadi cuando vamos al texto elaborado aprobado y remitido a este parlamento por el ejecutivo comprobamos que dista mucho de la posible discrepancia de criterios

queda de manifiesto que la respuesta del parlamento en fechas recientes a la propuesta presentada por el grupo socialista persiguiendo la eliminación de parte del articulado de la ley vasca de cooperativas no ha satisfecho a la señora sarasua pero no hay una diferencia de opinión objetiva

y el gobierno puedo garantizarle que entre los argumentos esgrimidos por el ejecutivo en fecha dos de julio y los manifestados por la directora de kontsumobide el veintitrés de septiembre en absoluto señora sarasua hay diferencia de criterios por eso mismo no podemos trasladarle tal y como usted solicita las razones la directora de kontsumobide pertenece a este mismo ejecutivo

la utilización del término arbitral por parte del ejecutivo en el contexto empleado no dista de ser un uso

en un proceso de búsqueda de soluciones en base a la labor encomendada a kontsumobide y las distintas opciones abiertas que manifestó públicamente su directora

recurrir y la vía de mediación que como usted conoce es la que estamos llevando desde kontsumobide arbitrala hitza erabiltzeak

la directora de kontsumobide solicitó a los grupos de esta cámara respeto y discreción respecto a este conflicto en el que kontsumobide está

de lograr la mejor solución para las partes y usted señora sarasua y se lo agradezco se mostró favorable a ello zuk dakizu

pero no somos partidarios de utilizar esta situación por lo que no vamos a entrar en este tipo de debates eskerrik asko

señor darpón

y nosotros también quedamos en que debíamos recibir información que a día de hoy no la hemos recibido pero bueno la recibiremos porque yo ya he hablado con la señora unzueta ayer solidaridad con los trabajadores

con todas las personas que están en el paro por supuesto y han perdido sus trabajos pero también con los afectados me hubiera gustado oírlo de su boca le quiero decir que es conocido que todas las sentencias emitidas hasta ahora por juzgados distintos en torno a este asunto han resuelto favorablemente para los ahorradores y ordenan la devolución del importe de las entidades comercializadoras hasta ahora del banco santander y del bbva el pasado martes además la audiencia provincial de álava

por primera vez condenaba también a la caja laboral que está en el mismo grupo que las entidades emisoras

no solo contra una de las comercializadoras sino contra una de las empresas emisoras como venimos advirtiendo desde el grupo socialista la vía judicial no es la más conveniente porque los jueces hasta la fecha mantienen un criterio homogéneo en defensa del consumidor en coherencia con otras resoluciones judiciales en toda españa referidas también a las preferentes y a las cláusulas

para qué me lo oiga decir yo no tengo ninguna duda de que nadie de esta cámara

tampoco para que no quede ninguna duda en cualquier caso como usted bien sabe

evitar nosotros estamos trabajando en un modelo de mediación como usted también sabe son miles de afectados y sin embargo en kontsumobide hay menos de mil reclamaciones

no parece lógico aferrarnos a cuestiones puramente de lenguaje para tratar de aflorar una cuestión

compromiso discreción y respeto y hasta la fecha lo hemos tenido esperemos seguir así eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna jarraian

eta kooperatibistei bi solicitar que las instituciones conjuntamente con el grupo cooperativo encaucen la situación actual

de la economía social y productiva de euskadi confiando

aplicará los principios de solidaridad que han caracterizado siempre al movimiento cooperativo hiru zentzu horretan honako hau adierazten dugu